buenas tardes señor lehendakari señorías el debate que eh bildu plantea en esta cámara

en el siglo pasado ya debatió sobre este asunto izquierda unida de aquel momento planteó el debate sobre el cultivo o no de transgénicos y su comercialización

tipo de cultivo en españa y trece en otros lugares especialmente en países americanos y este debate se planteó desde la moderación y el principio de precaución

efectivamente la experiencia era muy corta y algunos desconfiaban de las bondades que nos contaban de fuera el contexto del momento era complicado

que tenían alarmada a la sociedad tengo que decir

ninguna duda en aquel momento en el partido popular así lo manifestamos en esta cámara entonces y lo manifestamos en ahora y ahora con más razón

hoy las evidencias científicas nos han demostrado que estábamos en la postura acertada la justificación que eh bildu presenta en su iniciativa es un conjunto de barbaridades que no hay por dónde cogerlas rebatidas

en biotecnología todas rebatidas pero usted es impermeable a la ciencia a la investigación usted

dice por ejemplo y lo ha repetido hoy aquí que el cultivo de organismos modificados crea dependencia a los agricultores

que en mi familia que hemos hecho toda la vida agricultura tradicional todos los años comprábamos semillas qué problema tiene eso compras unas semillas que está certificada que es de calidad que está protegida

una buena producción y la mejor producción posible eso se hace

en la agricultura tradicional no sé si se entera por lo tanto son afirmaciones que son barbaridades

si precisamente por algo el bt es tan interesante

es porque la semilla ya está preparada y es inmune al taladro por lo tanto no hay que echar herbicida lo cual nos da una productividad

por lo tanto lo que usted dice aquí es falso sencillamente falso

en esta cámara pero usted no atiende usted sigue en su discurso erre que erre aburre a las moscas

también fue rebatido en esta cámara y le tengo que decir que después de más de veinte años de esta producción no existe ningún evento de contaminación ni en plantas ni en animales ni en humanos no sucede igual por ejemplo con los productos ecológicos ya que existen eventos de algunas concentraciones de micotoxinas que sí hay constancia de ellos

y yo quiero que se investigue y que se pueda avanzar en esos términos pero sí que hay eventos en agricultura ecológica y no

de organismos modificados genéticamente por lo tanto seamos nos atengamos a la realidad y a las evidencias científicas y a lo que día a día está demostrado señorías la base de la civilización es la agricultura que tiene

puede sacar alguna rentabilidad lo que hace primero es hacer una mejora genética con los medios del momento haciendo muchas pruebas supongo pero la agricultura que hoy tenemos es toda modificada genéticamente vale sin controles sin ningún control

sin ningún control como tampoco tiene la agricultura ecológica por cierto ningún control por lo tanto las modificaciones genéticas o transgénicos

se han hecho lo que se llama la biotecnología y la biotecnología

y también en la agricultura y está aquí y está para quedarse ya lo siento

porque usted no debate usted impone no debate no es permeable a la ciencia

no le importa nada siempre ha habido agoreros

ante las nuevas tecnologías fíjese se decía la luz eléctrica nos va a provocar la ceguera a todos pues todos estamos con la luz eléctrica aquí

se va a desintegrar oiga a cuarenta kilómetros por hora

siempre ha habido agoreros y probablemente los tiene que haber para que exista

le animo a que siga en su línea porque es importante y también que de vez en cuanto se manifieste la parte de la sociedad que no cree en la ciencia y en la tecnología y en los avances

a decirle que creo que está equivocado pero nada más neiker

en sus informes anuales habla de innovación agraria y dice que el reto en el país vasco es la búsqueda de alternativas productivas

en la realidad en la necesidad de la aplicación de la biotecnología para la obtención de productos de mayor valor añadido oiga neiker usted aspira y además hace muchas iniciativas

hable para que avance pues esto dice neiker en sus informes no sé si lo ha leído estará preocupado no no sé señorías existen planes de control de seguimiento para este tipo de cultivos y lo que resulta de estos informes es que el cultivo por ejemplo el maíz

único producto transgénico que se produce en españa es más seguro

y mire yo no me lo invento verdad la escuela técnica de superiores agrónomos

lo dice y lo afirma en sus informes por lo tanto

a estos técnicos especialistas que a usted

de contaminación un evento en la salud en las plantas en los animales que haya sido producido por los cultivos transgénicos no hablo por hablar dice que hay efectos negativos para la salud que se ocultan oiga que si los conocen póngalos de manifiesto

dónde se ocultan quién los oculta mire

los productores no necesitan que venga usted a protegerles necesitan que las administraciones propicien las condiciones necesarias para realizar su actividad en las mejores condiciones posibles poder ser más competitivos tener libertad de elección a la hora de elegir el tipo de producción

de elección que les da la directiva europea de coexistencia que la enmienda que ha presentado el partido popular es una copia exacta de lo que dice

entre producción ecológica convencional o cultivo transgénico y libertad al consumidor para elegir

oiga que no quiero que decidan ustedes por nadie que ya somos mayores que ya sabemos decidir por nosotros mismos que los productores lo que necesitan es que se les garantice la libertad de elegir por lo tanto

tengo que decir que nosotros vamos a votar gustosamente a la enmienda de transacción que no pero gustosamente no tengo ninguna duda porque nada de lo que proponen ahí

bien la comunidad autónoma vasca es una zona libre de cultivos transgénicos

y de los animales queremos que siga siéndolo así el grupo socialistas vascos apostamos por la agricultura ganadería alimentación

nos parece vital nos preocupa por supuesto la calidad alimentaria y vemos las necesidades de proteger a nuestros agricultores

de las contaminaciones cruzadas la utilización de pesticidas y fertilizantes químicos

o el despoblamiento de las zonas rurales son algunos de los problemas que afectan de manera decisiva a nuestro medio ambiente

el grupo socialista presentó una proposición no de ley para su debate en este pleno donde se instaba al gobierno vasco a regular legalmente la declaración de nuestra comunidad autónoma libre

el partido socialista llevó la iniciativa que fue aprobada nuestra preocupación es que no existen acuerdos con el resto de comunidades autónomas limítrofes para establecer pasillos libres

con el fin de garantizar la no contaminación de nuestros cultivos puede existir el riesgo de mezclas polinizaciones cruzadas muy difíciles o imposibles de controlar aunque

en la actividad agrícola para la prevención y así poder evitar estos riesgos y nos sorprende por eso el afán de quienes

saben la posición socialista con respecto al derecho a decidir ese que el lehendakari el señor urkullu dice no estar en sus prioridades

y nos lo encontramos en los transgénicos con todo el respeto es mezclar churras con merinas no sabemos si buscan

sobre el derecho a decidir o sobre la protección de nuestros productos y nuestras formas de entrar en una práctica productiva insto más allá de nuestra posición política sobre el derecho a decidir lo que nos propone es una demostración práctica

es en el enunciado no sirve para resolver problemas

capacidad para decidir sobre nuestros cultivos si en nuestro entorno no se limitan los transgénicos me pueden explicar ustedes cómo se evita que el polen del cultivo transgénico en castro

en viana o en hondarribi no alcanzan a los cultivos de muskiz

o gipuzkoa ninguna pega tenemos para reclamar más capacidad para regular sobre lo nuestro pero eso no va a ser

nos parece necesario que el gobierno vasco trabaje junto con el resto de las instituciones competentes también con las comunidades del entorno

y con la administración central en la materia y en la protección de la biodiversidad de los cultivos y el patrimonio genético de las semillas

y el patrimonio comercial que supone la política de calidad que unida a la producción tradicional de los productos agroalimentarios

la competitividad del sector vasco las condiciones locales no se utilizan medios externos por efectos contaminantes o por lo tanto se prescinden del uso de fertilizantes químicos

u órganos genéticamente modificados o transgénicos y en general de todo tipo de productos de síntesis no natural la agricultura ecológica

no es cuestión de oposición por oposición sabemos que la modificación genética puede tener ciertas ventajas pero a día de hoy lo que tenemos

sin lugar a la duda de las bondades de los transgénicos seis son las empresas que tienen todo el control de las variedades genéticas

bayer dupont pioneer entre otras multinacionales que dan al mundo las semillas

ellos mismos tienen farmacéuticas y alimentación científicos de ochenta y dos países del mundo denuncian los peligros

y marcan la preocupación por los peligros que presentan los transgénicos para la biodiversidad la salud alimentaria la salud humana y animal señalan su oposición en estos cultivos pues intensifica el monopolio cooperativo que las desigualdades e impiden el cambio

que pueda garantizar la seguridad alimentaria y la salud de todo el mundo debemos trabajar para demandar más apoyo a la investigación

a las familias de agricultores de todo el mundo y además

una normativa menos restrictiva para los productos modificados genéticamente

creadas artificialmente en estados unidos pero cuya comercialización no se está permitiendo de momento en europa de los diecisiete transgénicos aprobados con destinos alimenticios quince son resistentes a herbicidas y ocho son resistentes a los glifosatos los cultivos transgénicos resistente a los herbicidas

tóxicos en los alimentos y estas advierten según la organización mundial de la salud sobre

cuentan con los límites máximos de residuos de este herbicida permitidos en la alimentación los principales efectos sobre la salud aparición de nuevas alergias por la introducción de nuevas proteínas en los alimentos

tanto humanas como animales aparición de nuevos tóxicos en los alimentos

por un mayor uso de producción química en la agricultura disminución de la capacidad fértil causas de cáncer malformaciones congénitas

este es el contexto y en él no está de más ratificar que nuestro territorio

de transgénicos como ya se hizo a instancias socialistas

debemos tener todos la cautela y por ello si están de más maximizarlo de no llevar ninguna parte queremos que los transgénicos

defender el posicionamiento que tenemos queremos el máximo desarrollo de nuestra competencia para proteger a nuestros productos

por todas las vías en apoyo económico comercial y queremos que esta protección venga

por mucho que aquí no se plante ni se apoyen los transgénicos no podemos impedir que nuestros productos se contaminen que no se puedan poner puertas

volcaremos esfuerzos en asegurar que nuestro entorno el del futuro de euskadi

por todo lo expuesto hasta ahora mi grupo socialistas vascos defendemos una agricultura social y sostenible que garantice una alimentación segura sana

que promuevan la protección ambiental y el bienestar animal

por lo tanto después de lo ya dicho votaremos nuestra enmienda porque recoge la forma de seguir trabajando

y décimos que los controles que se deben hacer son los que se deben desarrollar es lo importante defendemos la agricultura la ganadería

y protegemos a la población en términos muy exhaustivos nada más muchas gracias

empecemos con didáctica los transgénicos o más ajustadamente nominados organismos modificados genéticamente son seres vivos

estas técnicas de ingeniería genética se han utilizado para intentar introducir nuevas características a los cultivos

en bastantes países ya se ha dicho sobre todo variedades modificadas en soja

a pesar de la ingente propaganda sobre multitud de funcionalidades introducidas en las variedades

realmente hasta ahora se han hecho variedades comerciales que incorporan exclusivamente dos caracteres

y la tolerancia a herbicidas realmente un ochenta y uno por ciento de los cultivos transgénicos del mundo

que no es lo mismo la mejora genética clásica pero no olvidemos que este modelo científico tan acertado y propiciado la mejora genética clásica manipula la evolución natural de los seres vivos también y los fuerza hacia características que de su antropocentrismo decide el propio ser humano

manipula directamente los genes y por tanto al revés que la mejora genética clásica

y sus efectos sobre los equilibrios naturales son despaciosos y por tanto relativamente más sencillos de atajar si en su caso

todo esto podría ser útil exclusivamente para ilustrar a sus señorías lo que ya es pero obviamente la intención sin renunciar a la ilustración va algo más allá sin ser radicalmente contrarios a la transgenia sí que nuestra virtud de la sensatez que la tenemos

de tales tecnologías creemos y defenderemos en el avance y la investigación en la indagación sobre adelantos en estas tecnologías de hecho más de un premio nobel creo recordar que los últimos príncipes de asturias

científicos que se dedican a la transgenia apoyaremos

en los posibles efectos que se puedan producir no tanto en la salud materia en la que creemos se trabaja con bastante seguridad

tras la brusca irrupción de variedades que puedan modificar comportamientos medioambientales de difícil interpretación

a partir de ahí y habiendo hecho una somera explicación global del artificio de la transgenia toca mirarse hacia adentro y pensar en nosotros en nuestros campos en nuestros agricultores y agricultoras y en nuestros productos autogobernuaren hasieratik

el gobierno vasco de la mano del pnv cómo no fue uno de los fundadores de la red de regiones europeas libres de transgénicos creo recordar el año dos mil cinco

es cierto que en aquella red se movían distintas regiones europeas

para desear ser libres de transgénicos era variada pero nos unía una reivindicación que era la de disponer de la competencia suficiente para declararnos libres de transgénicos sin depender de las decisiones de la comisión europea el gobierno vasco incluso llegó más lejos y aprobó en dos mil nueve un decreto sobre coexistencia que de facto prohibía los transgénicos en euskadi si bien es cierto que la ue dictaminó que había que derogarlo

el gobierno socialista lo derogó y ahí se acabó la historia

en la que autoriza a los estados miembros a prohibir de forma motivada la siembra y plantación de ogms autorizadas por la propia unión si la ue autoriza a los estados tal decisión

por qué no puede hacer lo mismo el estado a vida cuenta de que las comunidades autónomas tenemos diferentes modos de valorar los transgénicos y muy diferentes modos de efectuar políticas agrarias por mucho que el ministerio de agricultura se empeñe

ya que estoy aquí y aunque me reservo para la réplica algunos asuntos porque se me va a gastar el tiempo no puedo

dejar pasar lo que ha dicho la señora fresno sobre el derecho a decidir señora fresno creo que ha leído mal

lo que dice solicitar al gobierno español que la competencia y el derecho a decidir sobre autorización y prohibición sea del gobierno vasco lo mismo que hoy

que el derecho a decidir sobre cómo queremos gestionar las viviendas en euskadi sea nuestro lo mismo que ayer se le pidió que el derecho a decidir sobre cómo gestionar el fracking sea nuestro

hain zuzen ere para ir finalizando porque hoy por hoy el tema aquí traído no tiene más recorrido

entendemos desde el grupo nacionalista que sin rechazar de plano y de un modo genérico los alimentos transgénicos entendiendo que seguro que en otros lares puedan ser útiles

se debe ejercitar en su consumo o no en euskadi dado el tipo de agricultura por el que hemos apostado la siembra y plantación de variedades transgénicas quebraría

el trabajo de muchísimos años en el fondo y en realidad no se trata de prohibir o permitir se trata de asumir por nosotros y para nosotros una responsabilidad la responsabilidad del saber gestionar una nueva técnica y los productos que de ella se derivan

la aceptación de la responsabilidad no es la aceptación de una carga es la multiplicación de la oportunidad muchas gracias eskerrik asko

alimentos más sostenibles las semillas transgénicas en la agricultura ecológica yo le pediría que si todos los argumentos que usted nos dice nos ha dicho aquí

dice en este informe por lo tanto mire usted mismo

los datos científicos más recientes de análisis de los cultivos transgénicos y ecológicos

son unos como otros por lo tanto entendemos que la evidencia científica no justifica el rechazo actual de la agricultura ecológica a los cultivos transgénicos

cada día que pasa está más demostrado y es más evidente

pero es que lo dice coag un sindicato que es muy próximo a ustedes sindicato agrario

en la innovación y en la biotecnología lo contrario significa la defenestración y muerte del sector agroalimentario decían que en el país vasco no se cultivan transgénicos porque

de comunidad autónoma libre de transgénicos mire aquí no se cultivan transgénicos porque no es necesario cultivar transgénicos porque no es interesante esa producción aquí

eligen como producción interesante para su actividad y aquella declaración es bueno pues que ahí está de consumo interno de imagen y una cosa muy importante para tener un sillón en el comité de regiones europea de

para eso para vender imagen de país vasco no para otra cosa

en que se cultiven pues se cultivarán no pasa nada eso es imagen y nada más

antagónicos se complementan por lo tanto yo creo que si usted

a la agricultura a la ganadería y al sector primario en la comunidad autónoma

apoyar la iniciativa que nosotros presentamos que como le digo es lo que dice la directiva europea de coexistencia

a la hora de elegir el tipo de producción y libertad a los consumidores

por qué usted para poner en valor la producción el modelo que usted

tiene que prohibir los demás oiga no si tan bueno es su modelo y se forma por sí misma

su modelo tenga que prohibir los demás a ustedes les gusta excesivamente la palabra prohibir y les gusta excesivamente decirnos al resto

posible pues no existen otros modelos y son perfectamente compatibles

claro que sí se lo dijo la señora renobales en la comisión sí señor sí señor y mire yo lo único que

el derecho a decidir no es necesario en esa frase poner derecho a decidir porque claro si usted solicita la competencia sobre autorización

yo no quiero que usted decida por todos los productores de la comunidad autónoma yo quiero que los productores de la comunidad autónoma cada uno individualmente tenga derecho a decidir

no la quiero no la queremos como no la quieren los productores sea usted democrático

a cada productor de qué producción quiere elegir no tiene que decidir la administración vasca no no señor

es así y eso es lo que dice la directiva de coexistencia por lo tanto si tanto les gusta la normativa europea respétenla por qué no la quieren respetar por qué no quieren respetar la directiva de coexistencia qué les preocupa qué les molesta de esa directiva

vuelvo a repetirle sobre el derecho a decidir no es lo que nos trae aquí hoy venimos a hablar de los transgénicos venimos a hablar de las necesidades de las prácticas reales para resolver el problema lo vuelvo a repetir

sirven tener en plena capacidad de decidir sobre nuestros cultivos

no se limitan los organismos modificados genéticamente

con el resto de comunidades limítrofes para establecer pasillos libres de transgénicos y garantizar la no contaminación de nuestros cultivos estará usted de acuerdo conmigo que pueden exigir el riesgo de mezcla

polinizaciones cruzadas muy fácil que ocurra todo esto y yo diría imposible de controlar

sino según ustedes cuál es la solución sobre la protección de nuestros productos

no solamente contamina de manera irreversible al medio ambiente sino que es totalmente incompatible con otro tipo de modelos agrarios por lo tanto

es que no pueden convivir la agricultura tradicional ecológica y los organismos modificados genéticamente otra de las preocupaciones que tenemos

se tienen como objetivo bloquear cualquier iniciativa para etiquetar los alimentos modificados genéticamente los consumidores deben saber

y el porcentaje de la presencia de estos organismos modificados genéticamente los elaborados con aditivos transgénicos como harinas

a granel como la fruta y la verdura el pienso y cereales lo que no se etiquetan de segunda y tercera generación como la leche y la carne alimentados con piensos transgénicos dado el rechazo mayoritario de los consumidores a los productos transgénicos

ya que es necesario que los productos se deban especificar

algo que intentan evitar los fabricantes se debe garantizar que la trazabilidad

de todos los productos y transformaciones desde el campo a la mesa así como la agricultura ecológica

orgánica o biológica se basa en la utilización en exclusiva de recursos naturales de un modo sostenible y equilibrado

el sello oficial de la unión europea parte de otros del país

de las comunidades autónomas para garantizar la variedad de los contenidos por eso pedimos al gobierno de nuestra comunidad

con un mayor control etiquetado que garantice la protección de productos libres de transgénicos lo mismo que vele por la calidad alimentaria

en nuestra ganadería el gobierno debe realizar campañas

y dar a conocer qué son los transgénicos cómo se producen estos alimentos y qué consecuencias desarrollan en perjuicio de las personas pedimos que puedan tener la información suficiente para garantizar una alimentación sana segura y nutritiva pedimos al gobierno una mejor y necesaria investigación y control de biotecnología ingeniería genética y se haga con la máxima protección a la agricultura convencional y ecológica mi grupo el partido socialista defendemos y queremos

los agricultores no quieren producir cultivos nocivos tanto para la salud como para el medio ambiente sino contando con productos que les den garantías

por eso se deben adoptar medidas necesarias para seguir trabajando por una agricultura familiar y tradicional más sana muchas gracias eskerrik asko

el parlamento insta al gobierno vasco a solicitar ante el gobierno español que la competencia y el derecho a decidir sobre autorización o prohibición de transgénicos

podría ser quizás un error de redundancia al decir competencia y derecho a decidir

pero podría ser también la competencia y por tanto el derecho a decir sea del gobierno vasco y fíjese

no se ponga no no crea que yo soy transgénico ni que el texto es transgénico

hoy a la mañana este parlamento ha decidido ha tenido el derecho a decidir sobre cómo organizar la vivienda en euskadi y ayer este parlamento

solo que en estos dos temas hay como un planeamiento que no permitir el derecho a decidir que se llama tribunal constitucional que siempre planea por ahí

de tribunales constitucionales no hablamos del derecho a decidir genéricos que ya llegará porque

el grupo bildu y el nuestro defendemos modelos agrarios muy diferentes y lo hemos

también nos ponemos de acuerdo en algunas cosas y en esta nos hemos puesto de acuerdo se parece a aquella red de regiones europeas que antes he citado

había partidos había los verdes alemanes había demócratas cristianos italianos radicales y estábamos nosotros y nos movían distintas motivaciones

el derecho a decidir sobre los transgénicos y que no hubiera poderes superiores

muy determinante de hecho no permitía entonces que los estados se negaran a los transgénicos cuando ellos decidían y ahora en la nueva directiva sí están cediendo terrenos es decir en ese sentido nos hemos puesto de acuerdo

aunque se puede utilizar la referencia mundial y sí hay problemas de contaminación señora lópez de ocariz hay problemas de contaminación

en arroces transgénicos claro que hay problemas de contaminación y ese es uno de los problemas más serios para lanzarse a los transgénicos los hay los hay

las clases y colores mire usted apela fundamentalmente señora lópez de ocariz a la libertad nosotros hemos defendido aquí

y por eso la capacidad de decidir nuestra es por el modelo agrario que tenemos es un modelo de calidad e introducir los transgénicos sería acabar desde nuestro punto de vista con ese modelo de calidad

en plena precampaña electoral un proyecto de ley para prohibir en euskadi la plantación de viñedo que no sea de calidad que no sea de denominación de origen está coartando la libertad de un agricultor a que pueda plantar

no puede negar la evidencia y además vamos a estar de acuerdo con usted porque estamos defendiendo mercados estamos defendiendo una agricultura de calidad

vino sin denominación de origen de mesa

en plena precampaña electoral para ver si rascaba algún voto pero está ahí es decir que

organizando la sociedad y estamos defendiendo con una

estamos defendiendo que los agricultores que quieran hacer

el inconveniente que van a tener de que les puedan contaminar muchas gracias

una trama tan delicada lo que funciona bien no debe cambiarse en educación la estabilidad en el tiempo es lo que permite precisamente avanzar

logramos instalar una cultura de evaluación en el sistema educativo vasco con objetivos ambiciosos rigor en los datos un sistema transparente y fiable de medición de competencias que nos han permitido hacer análisis de los factores y variables

de explicación de los resultados el objetivo siempre ha sido desarrollar un proceso de evaluación con asunción de responsabilidades por parte de todos

en fin el sistema en su conjunto desde luego no era la primera vez que se realizaba una evaluación en el sistema educativo vasco pero sí fue la primera vez en la que pretendimos todos que los resultados llegaran a nivel de centro y de alumnos con evaluación externa del centro

jamás un ranking de centro se hizo público jamás ningún dato de centro de externalizó un reto extraordinario de carácter técnico

en su desarrollo pero que mereció la pena destacaré algunos elementos favorables uno nunca hasta ese momento el sistema educativo vasco

fiable sobre su situación informes de variables y factores investigaciones vinculados a variables específicas dos

madres patronales sindicatos consejo escolar de euskadi y tres conseguimos un buen instrumento de medición de competencias valorado positivamente por más del ochenta y cinco por ciento de los agentes educativos y ahora

cuál es el propósito de una educación cuál es el propósito de un sistema de evaluación naturalmente

la calidad de los resultados escolares mejorar los resultados escolares cómo lo hacíamos con una columna vertebral la evaluación diagnóstica con qué más con los subsiguientes planes de centro que salían de esa evaluación diagnóstica así

un plan comprometido en un objetivo concreto como era

de los resultados escolares un cinco por ciento un compromiso evaluable

que se nutría a través de las distintas referencias que íbamos obteniendo esto lo hemos hecho en las distintas administraciones y ahora cuáles son repito las razones de ese cambio cuáles son por qué el departamento de educación cuando tiene todas las fichas ordenadas sobre el tablero da un golpe al tablero y hace saltar las fichas de momento no conocemos razón para ese cambio ninguna porque la evaluación de tercero de primaria señorías es una evaluación que se corresponde exclusivamente con las competencias

tenemos razones sin embargo para el mantenimiento de la evaluación en cuarto daré la primera las evaluaciones internacionales más importantes aplicadas

se realizan en cuarto de primaria hay dos evaluaciones de carácter internacional que se realizan en primaria ambas impulsadas por la iea asociación internacional de la evaluación y que son el estudio

para las matemáticas y las ciencias ambas dos

cuando los alumnos tienen diez años nueve diez años de edad lo que se corresponde con nuestro cuarto de educación primaria y además

bien si no tenemos estas evaluaciones de cuarto de primaria

estudios comparados a nivel externo con europa y con el resto del mundo

no hay países a nivel europeo que realicen pruebas externas en la primera etapa obligatoria antes de cuarto de educación primaria

eurydice y la comisión europea titulado pruebas nacionales de evaluación en europa en su página veintinueve dice en europa la práctica más habitual es que las pruebas estandarizadas nacionales

nuestra educación primaria se realicen por primera vez en cuarto curso o en un curso posterior correspondiente

han de utilizarse para fines de seguimiento y control y no tienen no han de tener un impacto decisivo en la trayectoria posterior de los alumnos es decir lo que nosotros tenemos implantado en nuestro sistema

discrecionalmente señorías porque tenemos afortunadamente un instituto de evaluación que sigue parámetros europeos e internacionales

por lo tanto no existen países a nivel europeo que hagan las pruebas obligatorias en tercero en tercer nivel de esta etapa les daré una tercera razón en un sistema bilingüe como el nuestro en el que las lenguas las dos lenguas oficiales están tan alejadas filológicamente y lingüísticamente

en los niños y niñas se hace algo más tarde no podemos olvidar que incluso en los modelos de inmersión

en el modelo b apenas el veintitrés coma seis por ciento del alumnado de una lengua familiar euskaldun siendo el setenta y seis coma cuatro los que tienen el castellano u otras lenguas

lo que requiere que cuando llegan al colegio cuando llegan a la escuela el modelo de inmersión modelo b

de nuestros alumnos escolarizados tengan que fijar la lectura y la escritura en una lengua

lo que obviamente se corresponde con un mayor esfuerzo con una mayor necesidad de tiempo esto señorías es una razón muy poderosa para que la prueba estandarizada que no cualquier control que se puede realizar

pero que la prueba estandarizada se haga un poco más tarde es decir

de educación primaria esta es una razón muy poderosa entendemos técnicamente muy pertinente y que además nuestras sucesivas evaluaciones han dado como resultado que así deba ser pero aún hay otra razón que también quiero mencionar

ni desde un punto de vista educativo como acabo de decir ni técnico que justifique el cambio de cuarto a tercero de educación primaria salvo la pura

en una evaluación señorías en una evaluación es competencia exclusiva

cómo va entrando pero en una evaluación estamos hablando de la de tercero

competencia exclusiva de cada administración educativa con lo que se da que el producto el resultado que estamos obteniendo es verdaderamente

absurdo porque señorías cuando ciertamente cuando ciertamente más de doce de quince comunidades autónomas

nosotros con un movimiento con un movimiento absolutamente lomcerista más lomcerista que el propio que está abandonando el barco si no lo ha abandonado ya estamos en vez de ralentizando la maquinaria apurándola hasta el punto de

un cambio de la etapa de primaria dividiéndola en dos ciclos puede darse la circunstancia de que incluso

sigamos con una aplicación en primaria que señorías no sigue hoy nadie salvo el método montessori en la infancia por tanto

pido sentido común sentido de la propiedad no se pide no se pide en absoluto la insumisión

de fijar controles internos se hacen en tercero se hacen en segundo se hacen en primero pero una prueba estandarizada

y ha de seguir por razones bien poderosas porque queremos seguir manteniendo las referencias internas que hemos venido generando desde dos mil nueve y que no se pueden dilapidar y por referencias externas

es muy importante que el sistema educativo vasco siga resistiendo la comparativa con los sistemas educativos europeos e internacionales por todo ello señorías solicito el voto a favor de esta

que hemos transado entre el grupo bildu y el grupo socialista nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea zuzenketak aurkeztu dituzten

sailburu buenas tardes a todos estamos ante una nueva puesta en escena una nueva puesta en escena que da continuidad a ese empeño que algunos grupos mantienen desde hace ya meses

inútilmente todo hay que decirlo la ley orgánica de mejora de la calidad de la educación y hacerlo a la menor oportunidad lo han dicho aquí y lo han firmado incluso fuera

falta de diálogo que simplemente escondía antes y sigue haciéndolo ahora la verdadera naturaleza de sus intereses o lo mío o nada en nuestra opinión

ni siquiera sirve para la reflexión sobre la necesidad de cómo mejorar nuestro sistema educativo a través de un elemento de un instrumento relevante que proporciona la reforma educativa como es la evaluación del propio sistema la única obsesión que parece entender algunos es obstaculizar

por lo tanto quitémonos la careta hablemos de educación y expliquemos con meridiana claridad primero a las familias porque vamos

qué hay de malo en que tengan una información fiable y certera sobre de sus hijos qué tiene de malo que cuenten con información de su centro educativo y del resto de centros no hay nada malo todo es positivo y además es preciso que conozcan también si su centro

o cuáles se aproximan más a esas expectativas digamos también a los propios centros educativos que la información que les puede proporcionar las evaluaciones

de la autonomía que les concede esta ley expliquemos también a los profesores los más apreciados guías de los alumnos que con las evaluaciones van a disponer de un eficaz instrumento para detectar y corregir las posibles deficiencias de los alumnos y también del sistema y que gracias a ellos se les podrá conducir hacia el éxito como la propia proponente nos

iniciativa nos permite disponer de una información longitudinal

el impulso de procesos de mejora permanente y el desarrollo de investigaciones educativas por lo tanto debemos explicárselo también a la propia administración a la que la información procedente de las evaluaciones les permitirá actuar en aquellos centros que no cumplan

pero también podrá detectar aquellas zonas que debido a su especial dificultad necesitaran planes de actuación preferente

que por primera vez se da la oportunidad a la igualdad de oportunidades en el acceso a una educación también de calidad de verdad que algunos

que esto es malo para el sistema y malo para los alumnos la realidad es que la dejación de funciones de algunos gobiernos por un lado y también

han hecho que nuestro sistema educativo haya desdeñado durante años una de las medidas más valoradas y más eficaces en la búsqueda de una educación de calidad

por cierto una mejora notable en los resultados

que seguro que ustedes ya conocen pero vamos a compartirlos

veinticuatro de los treinta y cuatro países de la ocde disponen de una prueba externa y estandarizada de carácter

nacional diecisiete países en europa disponen de esta prueba también con carácter nacional

como otros informes internacionales señalan que aquellos países que disponen de pruebas externas y estandarizadas

y estandarizadas mejoran su rendimiento dieciséis puntos por ejemplo por ello hoy

un poco de rigor y seriedad ante una de las modificaciones más importantes y necesarias del sistema educativa me alegro que a la señora celaá le haga gracia

sus objetivos nosotros no vamos a negar

que los resultados de la educación en el país vasco responden a ese criterio a esos datos aportados por la consejera

y deben de reconocer debemos de reconocer que tenemos que mejorar que podemos mejorar mucho y que por lo tanto queda mucho por hacer en un proceso constante de mejora y de crecimiento otras comunidades más molestas en renta y presupuesto

y en lectura nos supera madrid nuevamente y castilla y león somos

además con lo que gastamos por alumno en esta comunidad no deberíamos de conformarnos con estar simplemente por encima de la media española con lo que gasta el país vasco debería obtener unos resultados en los informes pisa que nos deberían de situar a la cabeza de las regiones ricas en los países miembros lo que lamentablemente aún no es así por lo tanto no estaría mal que al menos en esta parte de las pruebas de evaluación

y en ignorar la aplicación de una ley de obligado cumplimiento van a convertir la educación en nuestra comunidad autónoma en un reducto de resistencia y de parálisis

calidad y excedencia hacia la que camina el resto

aquí se está hablando de cosas distintas como si fueran una sola aquí se está mezclando un poco de todo una cosa son las evaluaciones internas que realizan los propios centros

las evaluaciones de diagnóstico se plantean para conocer la situación de partida del proceso de aprendizaje de abordar a cada caso y poder diseñar así una intervención educativa

en cambio las evaluaciones finales las reválidas tienen carácter de verificación

y en base a ellas se realizan tomas de decisiones de tipo eminentemente administrativo como podría ser la superación de un nivel de una etapa la promoción o una titulación eta ministerioaren errebaliden helburua kontrola da

el gobierno vasco ha explicado una y otra vez que la prueba que se lleva a cabo únicamente en beneficio de la calidad de la enseñanza y de nuestro alumnado a través del desarrollo del modelo educativo pedagógico elaborado dentro del plan heziberri dos mil veinte

no afecta al expediente académico del alumno o de la alumna es decir no es una evaluación con consecuencias académicas es una evaluación que se realiza internamente

abordamos la evaluación de tercero de educación primaria teniendo en cuenta principalmente dos elementos

por tanto creo que hay que trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad a las familias y a toda la comunidad educativa gure zuzenketa oso argia da

gracias a las evaluaciones además de detectar carencias y dificultades hemos llegado a obtener entre otros las claves de los centros de un alto valor añadido

sino para conocer dónde nos encontramos en qué situación de desarrollo se encuentra cada alumno y cada alumna y a partir de ahí poder mejorar el proceso de aprendizaje de cada uno de ellos y de ellas

la verdad señor sémper es que usted me ha parecido simpático

de motores a reacción que ya no sé ni si existen

increíble pero increíble que usted llegue a afirmar que

pero oiga si es que eso es lo que ustedes están haciendo o lo suyo o lo de nadie la prueba está

era una legislación compartida pactada pactada la suya no la suya no pero es que luego además se ha equivocado usted completamente de música de tango

para allá tenía que rellenar el papel en fin oiga que estamos hablando de evaluaciones

que además cuyo resultado se llevaban alumno a alumno familia a familia con más de cien mil expedientes

dese cuenta dese cuenta más de cinco evaluaciones con todo su desarrollo

sobre todas las variables que existían en esas evaluaciones de los resultados de esas evaluaciones

para tener dos años más para plan de mejora de centro confidencial no rankings de centros públicos no

otros dos años para corregir en el centro con planes de mejora de los centros todo eso hacemos porque lo hemos hecho este año también

no me gusta esa costumbre hay que mejorarla pero oiga hemos hecho cinco veces tenemos consolidada la cultura de la evaluación y ahora de pronto eso

a nuestra querida amiga jone y a la señora berriozabal qué le voy a decir pues que lamento mucho que usted haya tenido que entrar en este debate

se ha ido del debate usted se ha ido del debate porque no podía masticar ese debate no lo podía masticar en primer lugar la primera mitad el señor sémper se ha pegado a su tacón luego no pero efectivamente quedaba partido popular partido nacionalista vasco juntos

que salir de este debate mezclando un poco de todo mezclando todo

porque para mejorar la educación como si lo que hubiera en cuarto y en segundo fuera para empeorarla ustedes hacen en tercero para mejorar la educación

con una prueba piloto experimental protestada por todo el mundo

ni siquiera en una muestra discrecionalmente seleccionada de treinta centros cuya prueba solo ha sido pasada por algo más de la mitad dígame usted qué se puede deducir de ahí que sea solvente mire oiga

es mantener el sistema propio de evaluación ese es nuestro sistema y claro el que considere que da lo mismo ponerlo en cuarto que en tercero es que no ha oído nada

una prueba estandarizada a los diez años o hacerla a los ocho no ha oído nada

y es que el que habla de educación si no habla de evaluación solvente de evaluación bien consolidada no está hablando de nada porque no mejorará la calidad y quiero terminar con algo que me produce una preocupación importante acaba de salir señorías el euskobarómetro que me lo acaban de entregar

euskobarómetro afirma que en solamente de febrero a abril

por la educación por nuestro sistema educativo se ha incrementado en tres puntos esto sí señorías que es para pensar esto es para pensarlo y es que efectivamente volvamos por favor a ordenar las piezas tenemos un excelente sistema educativo por favor no lo dejemos

no lo derrochemos porque la lomce señor sémper

apunto apuntito de terminar de morir como usted bien sabe de quince o de diecisiete comunidades autónomas doce ya se han constituido

por tanto ya sabemos que es una ley orgánica esperaremos a las generales

pero lo único que ha entrado en vigor es el tercero de primaria responsabilidad exclusiva competencia exclusiva de las comunidades autónomas y yo no quiero que esta comunidad autónoma

nos deje irnos deje que se vaya el niño por la bañera con las evaluaciones de

señorías en fin mantengan lo que tenemos cuando es bueno

señora celaá yo tengo que darle las gracias muy sinceramente porque uno siempre aprende escuchándole a usted y es una oportunidad para todos los parlamentarios de esta cámara tener la oportunidad de escucharle a usted en esta tribuna

incluso usted a mí a veces la mayoría de las veces me lo parece también

que usted es perfectamente capaz de hablar de motores de física cuántica e incluso ilustrarnos o sea que no se corte seguro que es capaz de hacerlo señora celaá no le han protestado todos los centros educativos no en la pública

si va usted a aportar información y aportar datos permítame que humildemente le corrija

incorporación de la evaluación en tercero y en españa

ha sido siempre socialista siempre en la historia democrática de españa

que no ha sido aprobada por un gobierno del partido socialista la primera la única ley

esas leyes que seguro que han contribuido en muchas cosas en positivo seguro pero que

porque no podemos mantener un sistema educativo con un veinticinco por ciento de fracaso entre el alumnado eso seguro que hasta usted

pero al final de lo que estamos hablando aquí es de adelantar la evaluación

a tercero y cabría que preguntarse por qué en aquellos países en los que se produce en tercero

por eso no parece una razón suficiente de peso porque insisto allí en los países de la ocde donde se han adelantado o no pero donde tienen la evaluación de tercero o el equivalente

triunfa y da resultados positivos la argumentación suena escasa porque no aporta más información que es porque yo lo valgo

no es un argumento suficientemente de peso muchas gracias eskerrik asko sémper jauna amaitzeko

la posibilidad de detectar lo antes posible las dificultades para la comprensión y expresión oral para la lectura la escritura así como para el desarrollo de los procedimientos

correctoras de la forma más temprana y preventiva posible hortaz oinarri pedagogikoa izan badu euzko abertzaleak

y la señora celaá tiene dos preocupaciones fundamentalmente una tiene que ver con la continuidad de la serie de datos de las evaluaciones de diagnóstico

si así fuera usted hubiese aceptado la propuesta que le hemos hecho llegar que contemplaba el seguir realizando evaluaciones de diagnóstico a una muestra representativa a los alumnos de cuarto de primaria y segundo de secundaria que

sobre la situación de nuestro sistema educativo por tanto ese argumento no nos sirve y

que le preocupa que según en qué cursos se hagan las evaluaciones no se dispone de tiempo suficiente para elaborar e implementar los planes de mejora en los centros entonces

a ver si usted me podría decir en qué curso usted entregó la información obtenida de las evaluaciones que había llevado a cabo en el propio curso para poder implementar cuanto antes

que usted jamás entregó los resultados con tanta celeridad como para poder implementar los planes de mejora con inmediatez guk

bidea erraztu egin izan diote guztionak ziren ondasunak beregain hartzeko es evidente que existía un problema cuando la ley hipotecaria

de supuesta democracia no se eliminaron ciertos derechos que existían para premiar la inestimable ayuda de ciertos sectores de la iglesia en el mantenimiento del nacional catolicismo fascista español es evidente que existía un problema cuando en el noventa y ocho

se equiparó a la iglesia con cualquier entidad pública y se le permitió hacerse con propiedades de manera absolutamente injusta e irregular

no fueron un problema hasta que desde los pueblos de nafarroa empezaron a denunciar las expropiaciones es evidente que existe un problema cuando estamos a dos mil quince y seguimos sin saber

ha podido hasta este mes en el que se modificó la ley hipotecaria continuar libremente con este expolio agerikoa da arduradunak egon badaudela

abizenekin no todo es culpa de la iglesia existen responsabilidades políticas evidentes y no solo del gobierno ultra católico

sino de todos aquellos gobiernos que han permitido y permitieron que esta situación pudiera darse y continuarse en el tiempo

el escándalo protagonizado por la iglesia católica con la inmatriculación de al menos son datos de nafarroa todos ellos mil ochenta y siete bienes e inmuebles ochocientos cincuenta y uno lugares de culto y doscientos ochenta y seis

y hasta frontones todo se produce con la modificación del artículo cinco del reglamento hipotecario llevado a cabo mediante el real decreto

de cuatro de septiembre realizado durante la primera legislatura de aznar

que aparte de modificar cosas no modificó los artículos doscientos seis de la ley hipotecaria y trescientos cuatro de su reglamento claramente preconstitucionales y que son los que facultan a la iglesia para llevar a acabo tales

ha sido que ya les pertenecían a la iglesia desde tiempo inmemorial

al hecho previo de su propiedad el reino de los cielos no es de este mundo nos dicen

que no les ha pertenecido y por lo que nunca han trabajado para conseguirlo

así lo ratifican los libros de actas y cualquiera que se acerca a los archivos municipales parroquiales y notariales descubre de inmediato quién y cómo decidió levantar iglesias ermitas cementerios o casas de los curas aparece cuánto costó

o de la virgen evidentemente ni los obispos ni el clero han tenido un sistema de producción capaz de generar y justificar la construcción y mantenimiento de todos esos edificios

y las primicias de los vecinos y vecinas y es que como ha ocurrido siempre para que unos vivan como dios

debe existir un poder que mantenga sus privilegios pero volviendo al tema muchos de esos lugares contienen infinidad de obras artísticas
tallas isiltasuna mesedez de incalculable valor material artístico y patrimonial la casi totalidad de sus facturas están acreditadas
archivos correspondientes eso también le pertenece a la iglesia católica las diferentes épocas políticas

franquismo no modificaron prácticamente esa especie de limbo jurídico en el que se encontraban esos bienes públicos colectivos

la plaza el frontón el cementerio o la iglesia

y treinta euros el arzobispo de nafarroa procedió a inmatricular prácticamente todo desde sencillas ermitas hasta santa maría la real de uxue san saturnino o las catedrales de tutera y de iruña aduciendo contra la evidencia histórica que le pertenecía desde tiempo inmemorial no sabemos si se refería a él o a su alma inmortal la pretensión del derecho de propiedad de la iglesia

las consagraciones episcopales para sacralizar unos espacios con el fin de celebrar el culto religioso

son expresiones de rango y significado eclesiástico pero no constituyen título de propiedad alguno por lo menos en este mundo

aunque el punto de hoy esté muy relacionado con cuestiones de fe nosotros y nosotras no creemos que vamos dejar este asunto a la buena fe de la iglesia y a su cumplimiento del séptimo mandamiento el de no robarás por ello presentamos esta iniciativa

en la defensa del patrimonio público queríamos que se revertiese en caso de que así fuera las propiedades usurpadas al patrimonio público por parte de la iglesia católica queríamos defender y proteger aquello que era propiedad de los pueblos del pueblo y de nadie más por ello presentamos la iniciativa en la que hablábamos

hoy hemos podido llegar a una transacción con el partido socialista de euskadi con el partido nacionalista vasco paso a leerles el acuerdo que hemos alcanzado primer punto el parlamento vasco insta al gobierno vasco y al gobierno de españa solicitar con urgencia

el listado de todas las inmatriculaciones y datos correspondientes realizados por la iglesia católica en la comunidad autónoma del país vasco desde la entrada en vigor de la constitución española

a que se refiere el punto uno elabore un informe definitivo en el plazo de seis meses en el que se contengan todos aquellos bienes que desde la aprobación de la constitución han sidoinmatriculados a favor de la iglesia católica y las inversiones públicas realizadas

en esos bienes ese informe será enviado a las administraciones públicas afectadas y al parlamento vasco con el fin de facilitar la recuperación de la titularidad que corresponda

punto y último el parlamento vasco insta al gobierno vasco conjuntamente con las diputaciones forales a prestar a las entidades locales de la comunidad autónoma del país vasco la información jurídica e histórica relativa al origen y derechos de su patrimonio público así como apoyarles activamente en la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la iglesia católica

muchas cosas quedan en el aire con esta transacción como la necesidad de declarar inconstitucionales los artículos doscientos seis y doscientos siete de la ley hipotecaria

de defensa del patrimonio de nafarroa que hoy aquí hemos llegado a un buen acuerdo

no creo que nadie hoy aquí pueda defender el expolio de bienes públicos

lo realice la mismísima iglesia católica eskerrik asko

arratsalde on guztioi bueno pues efectivamente hablamos hoy de una situación especial que ha sido inscrita por el proponente

y hablamos sobre todo de una situación contraria a los principios democráticos más evidentes

porque especialmente la situación que teníamos atribuye a la iglesia católica el tratamiento de administración pública y le da por lo tanto potestad para inmatricular para registrar como propios

fuera una diputación aquellos bienes para los cuales no tienen

puede registrarlo como propios eso

la semana pasada con la aprobación en el congreso de los diputados de la modificación de la ley hipotecaria y del catastro y en eso ha tenido que ver

dos cosas fundamentalmente una el papel relevante del partido socialista por lo que voy a comentar

y otro el clima social unido

impulso político que ha sabido representar en este caso el partido socialista de que hay cosas que no es que sean anacronismos sino que son inaceptables por antidemocráticas porque vulneran la separación iglesia y estado que no tiene nada que ver

no sea una institución respetable y respetada por supuesto sino con la separación de iglesia y estado que ya está bien y esta vez por lo menos respecto a esto hemos zanjado definitivamente decía que el partido socialista para corregir esta situación presentó en el congreso tres enmiendas aparte de otras pero tres referidas a este tema una para evitar que

de manera que se eliminara el artículo doscientos seis de esa

se ha aceptado ha habido otros grupos que lo han apoyado y sobre todo ha habido una gran presión como supongo que el representante del partido popular porque nos conocemos y le estoy viendo al señor damborenea va a decir pero si es que tienen mayoría absoluta

pero es que en el proyecto de ley que salió del gobierno iba ese artículo y si se quitó tarde fue por una enmienda del partido socialista que apoyó una presión social y política que resultó al final inaceptable para el gobierno segundo

impedir la prórroga de esta situación porque en ese proyecto de ley también en una disposición en la quinta iba que la ley empezaría

casualidad para el asunto de la iglesia al cabo de un año con lo cual se da un año para que aquellos obispos que lo desearan

de aquellos bienes para los que no tienen ningún título de propiedad tardó en quitarse pero eso también al final se eliminó de la ley porque era impresentable

y la tercera se refería a un procedimiento para reparar el daño se pedía que el gobierno de españa hiciera un estudio para conocer la situación en la que aquellos bienes que

la propiedad por parte de la iglesia pudieran ser recurridos por el gobierno de españa para reponer la situación original de bien de uso público que el uso público los bienes de uso público son imprescriptibles

a ser propiedad de la iglesia católica y menos de esa manera pues bien esto no fue aceptado por el partido popular es decir el gobierno no quiere por un lado conocer la situación de algo que

no quiere hacerse cargo como correspondería a un gobierno que quiere reponer una situación antidemocrática y que vulnera derechos nada menos que de los distintos

instituciones del mantenimiento de templos cementerios y otros que no son de uso

que el mantenimiento colectivo de los ciudadanos a lo largo del tiempo que estén ahí pues el gobierno no ha querido reponer esa situación no quiere ser quien una vez conocida la situación recurra

no hace falta y se niega a hacerlo esa es la posición del gobierno actual

quiero dejar bien claro que los socialistas no somos contrarios a que la iglesia inmatricule bienes pues solo faltaría como cualquier entidad

aquellos para los que tenga un título de propiedad como todo el mundo pero que no

aquellos que son de uso público que para los cuales no tiene un título de propiedad esa es la diferencia bien clara como para los demás es pura constitución y decía que es verdad que ese artículo es inconstitucional por partida doble por un lado

dieciséis que en ninguna confesión tendrá carácter estatal y sin embargo le han dado tratamiento de administración pública agravado porque en el noventa y ocho

la posibilidad de inscribir como propios los edificios de culto que hasta ese momento eso había estado exento lo que no había hecho franco se hizo en el noventa y ocho bueno en fin al final

con la tramitación de esta ley pero queda la reparación de lo que está mal sobre todo y para eso en la transacción de hoy entre el partido nacionalistas vasco bildu y los socialistas

unas cosas muy sencillas que tanto el gobierno vasco como el gobierno de españa pidan a los colegios de registradores de la propiedad que envíen los datos de inmatriculaciones

que luego se apoye a aquellos ayuntamientos que quieran recurrir por vía judicial aquellos casos que sean inadecuados porque necesitan apoyo de las instituciones sobre todo los ayuntamientos más pequeños de las instituciones más grandes como las diputaciones o el gobierno vasco y queremos

sino como algo que le da conexión con la ciudadanía

en sintonía con los tiempos y en definitiva

desde una visión global tratar de identificar un daño que es evidente que no se perjudica ninguna institución

a aquellos a los que se les ha quitado sin ningún título de propiedad que lo permitiera bienes que eran suyos por tradición porque el uso para el culto no da título de propiedad a ninguna institución

lo dan otro tipo de documentos y para acabar por si alguien cree que en euskadi no hay casos yo he preguntado en el colegio de registradores es decir que nadie me diga que no se puede pedir en fin

y es verdad que lógicamente no me han dado un detalle individual de cada uno de los casos

desde mil novecientos noventa y ocho que es el dato que me han dado se han hecho cuatrocientos veinticinco inmatriculaciones con un posible error del siete por ciento porque hay un siete por ciento más de derechos que de fincas es decir hay fincas en las que

dos bienes por lo menos dos bienes la iglesia que puede ser una capilla y un cementerio o un frontón y pero del orden de cuatrocientos inmatriculaciones desde el noventa y ocho
la iglesia en euskadi luego sí hay tema que abordar y nada más gracias eskerrik asko reyes jauna